martínez andrea buenos días hay que justificar a la población
a los vascos por qué con la que está cayendo tenemos la televisión más cara por habitante de españa

lo cierto es que e i te be tiene todas las herramientas para ser una referencia en el mundo de los mas media y sin embargo la situación por desgracia no es así

una circunstancia que hace que los principios fundacionales de la televisión en los que tanto insistieron mis docentes durante la carrera de periodismo objetividad veracidad e imparcialidad sean un añadido ornamental que nada regulan que nada valen

independientes que puedan acceder al cargo en relación con sus méritos y con su capacidad con el fin de que la programación no se ciña a los intereses partidistas de cada momento

aquí también desde el escaño nuestra posición conforme o relativa a la actuación de los que hasta ahora vienen siendo los dirigentes y los responsables de la radio televisión pública de la e i te be es una posición crítica no lo ocultamos y además

nosotros creemos y además vamos a tener sobre esto una interpelación al consejero también de cultura como máximo responsable de última instancia

de suficiente autonomía reconocida por la ley pero nosotros pensamos que

pensamos que una etb en la que exista realmente una voluntad de constituir una televisión de todos para todos que

no tan solo la pluralidad sino también el pluralismo es posible sobre esto como digo nos extenderemos en otro momento aquí lo que se está discutiendo ahora es en lo relativo

y los dos grupos que apoyan al gobierno y han llegado a un acuerdo y han presentado

que el resto de grupos sobre todo el nuestro nos hemos enterado por la prensa no nos han consultado no ha habido tampoco un proceso de selección previa

que es lo que nosotros defendemos para este tipo de instituciones particularmente para algo tan sensible

existe por otra parte en este parlamento hay una proposición no de ley que tiene que ser todavía discutida en la que además se iba a discutir la necesidad

que es lo que nosotros defendemos también y vamos a defender nosotros por tanto tenemos una posición crítica

que los dos grupos han escogido pero sí que tenemos una posición muy crítica y por eso nosotros vamos a votar en contra creemos que esto tiene que hacerse a través de un concurso público

y que la etb esté gestionada por no solo un profesional de la materia sino sobre todo una persona experta con las máximas garantías

pero hombre la independencia respecto de los dos grupos o del partido sobre todo

que evidentemente no es así por eso nuestro voto va a ser en contra gracias señora presidenta eskerrik asko gordillo jauna elkarrekin podemos taldeko ordezkaria

una ponencia para la reforma integral de e i te be y es verdad que

tampoco se han materializado nada nosotros décimos que no a este nombramiento pero advirtiendo que nosotros no tenemos

aldekoa que es al final a quien se le está proponiendo lo que sí que ponemos en cuestión es el procedimiento que se pretende utilizar

que no existe a día de hoy nada que permita tomar una decisión en el seno del parlamento vasco respecto a la idoneidad

ninguna propuesta ni ningún proyecto ni ninguna memoria respecto a lo que pretende hacer él y

público los próximos años consideramos que e i te be sufre un exceso de politización

nosotros y nosotras el último sociómetro que abordaba la cuestión de la politización de la e i te be o si es o no un ente partidista ya

como por parte de la propia ciudadanía que lo valoraban de ese modo un ente

hacia el partidismo consideramos que es necesario establecer un mecanismo de elección del director o directora de e i te be que sea por concurrencia y

proyectos para la reforma de este ente algo

en los próximos años y también consideramos que

ya que aquí no vamos a tener opciones de conocer el proyecto que plantea ante en la comisión

lo que pretende hacer para los próximos años ya digo y vuelvo a reiterar

el proyecto estratégico del director de e i te be que a día de hoy o en estos momentos vamos a tener que decidir si es o no el futuro director no conocemos cuál va a ser su política en la transparencia en las adjudicaciones de programas de las productoras no sabemos si va a renovar el contrato programa de e i te be

no sabemos qué tipo de relaciones va a mantener con la representación sindical del ente que hasta la fecha ha sido desde luego muy nefasta esa política de diálogo

y por tanto nuestra posición en estos momentos es la de votar en contra el nombramiento por el procedimiento que se ha seguido eskerrik asko eskerrik asko soto jauna

sí gracias presidenta egun on guztioi señorías buenos días

fundacionales de e i te be que se recogen concretamente en el artículo tres de la propia ley y singularmente

al respeto a la defensa y promoción de los valores típicos

y en el estatuto de autonomía el respeto a cuantos derechos reconocen la constitución y el estatuto de autonomía el respeto al honor singularmente el derecho a la intimidad y a la propia imagen defendemos la protección y promoción de la juventud y de la infancia y la promoción de la cultura y la lengua vasca

a nuestra televisión como un servicio público esencial

seguimos compartiendo su consideración de instrumento capital para la información

así como medio fundamental de cooperación con nuestro propio sistema educativo y de fomento y de difusión de la cultura vasca teniendo siempre muy presente el impulso y desarrollo del euskera en este sentido en la medida en que seguimos comprometidos con todos estos principios rectores entendemos que hoy corresponde dar un voto de confianza a la nueva dirección y por lo tanto esa es la razón del voto favorable del grupo parlamentario socialista

asusten señorías que voy a terminar rápido corresponde decir que a nuestro juicio atestigua un perfil gestor

parece que resulta indicado para abordar los retos pendientes del ente tales como avanzar en digitalización y también avanzar en su modernización y adaptación a una realidad cambiante en el plano mediático influido fundamentalmente por la penetración de las redes sociales entendemos también que es un profesional de la comunicación que ha trabajado tanto en radio como en televisión de manera que conoce sobradamente el sector también

una dirección de equipos por lo que entendemos que se le supone experiencia para gestionar plantillas y organizar trabajo

ha demostrado un talante abierto y conciliador y por lo tanto

con la plantilla y también con este parlamento y con todos los grupos

finalmente efectivamente será el responsable de materializar y aplicar esa reforma en la que estamos trabajando en el parlamento en los últimos

es un deseo de todos pero no podemos confundir aquí términos y debates si es que a alguien

por esa línea lo que ahora hacemos es elegir a un director general y esto es una cuestión instrumental y lo hacemos cumpliendo con el marco normativo actual que es el que establece la mayoría necesaria como

otra cosa es que en un futuro y espero que sea próximo hagamos la reforma que dejamos pendiente con la finalización de todos los trabajos de la ponencia y establezcamos una nueva mayoría cualificada para elegir a sucesivos del ente u otro mecanismo de designación la nueva norma en la que trabajaremos esta legislatura así puede establecerlo

del ente y desde este momento tendrá entre sus funciones trabajar en lo previsto en nuestro acuerdo de gobierno concretamente en el acuerdo firmado entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi avanzar en esos retos pendientes para consolidar

es un reto importante en el que se le presenta de aquí en adelante así que le deseamos acierto en el ejercicio de su responsabilidad

labur geratuko zaizkidala mire creo que cometen un error

bale creo que cometen un error criticar el nombramiento de una persona antes incluso de conocer los resultados de su gestión es un error estratégico

para los errores futuros que pueden llegar no sé si llegarán pero que podrían llegar ustedes cuando lo critiquen me lo están poniendo a mí me lo están poniendo a mí tan fácil para venir aquí y decirles

señor soto ha hablado usted de un exceso de politización me sorprende me sorprende realmente que hablen ustedes de un exceso de politización porque mire le voy a leer las no tenía yo a podemos por un partido especialmente escrupuloso con la gestión de los medios

de una persona a ver si la conoce lo que no puedo entender es que en canal sur no haya ninguna diferencia entre cuando gobernaba solo el psoe y cuando gobierna el psoe con izquierda unida si el gobierno depende de ti tú tienes que exigir un mínimo de horas eso vale más con todos los respetos que la consejería de turismo para ti la consejería de turismo dame los telediarios por lo menos uno de los dos

en los principios que respeta podemos a la hora de gestionar la radio televisión pública no se basan precisamente

porque mientras ese procedimiento siga siendo el que es este parlamento tendrá que acogerse a él si ustedes quieren cambiarlo tráiganlo se debatirá los grupos tendremos nuestras opiniones

es una persona dialogante capaz de hablar con el resto de grupos y además tiene una acreditada experiencia como gestor de sociedades públicas y creemos que lo va a hacer bien

anticipado el objeto de la norma que se desea aprobar

a tres aspectos relacionados con su contenido función y significado nada de ello les será ajeno ya que el propio proyecto ha sido anunciado de manera oficial en esta sede la pasada semana en primer lugar a las razones que han motivado la elaboración y aprobación por el gobierno de una disposición de esta naturaleza

el concreto contenido del proyecto de ley sometido a la consideración de esta cámara y por último en tercer lugar al procedimiento seguido para la aprobación esto es a su tramitación en lectura única directamente ante el pleno

el vigente artículo diez de la ley trece barra dos mil diecinueve de veintisiete de diciembre por la que se aprueban los presupuestos generales de la comunidad autónoma de euskadi para el ejercicio dos mil veinte determina el límite máximo del endeudamiento a largo plazo de la administración de la comunidad autónoma de euskadi dicha limitación

por tributos concertados para dos mil veinte aprobadas el consejo vasco de finanzas públicas en su sesión

del diecinueve y con los acuerdos alcanzados en materia de estabilidad presupuestaria

al amparo de lo expuesto en la ley de concierto económico que establecieron

sin embargo nada descubro al decir que la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia internacional ocasionada por

un mayor gasto en servicios especialmente afectados por la pandemia así como una menor recaudación de los tributos concertados en efecto las previsiones de cierre de recaudación por tributos concertados para el año dos mil veinte aprobados en consejo vasco de finanzas públicas celebrado

con respecto a lo estimado inicialmente en consecuencia la preliquidación

de las diputaciones forales ha estimado una cifra inferior

a las consideradas en los ingresos del presupuesto del ejercicio veinte

la comisión mixta de concierto económico en la sesión celebrada el treinta de septiembre de dos mil veinte ha acordado la revisión de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública estableciendo respectivamente unos porcentajes de dos coma seis por ciento y del dieciséis coma tres por ciento del pib de la comunidad autónoma

entendidos como tasas de referencia para el presente ejercicio dos mil veinte al haberse suspendido las reglas fiscales para el periodo veinte veintiuno los presupuestos generales de

deberían ser coherentes con el nuevo escenario descrito de manera que contribuyan a paliar

y a impulsar la recuperación y dinamización de la economía vasca sin prejuicio de mantener el equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos aprobados en consecuencia

acordados como tasas de referencia para la comunidad autónoma de euskadi para el ejercicio dos mil veinte

de la comunidad autónoma y el efecto de superávit pendiente a compensar

diecinueve que asciende a trescientos sesenta y uno millónes de euros y que se aplica de hecho ya se ha aplicado para financiar el déficit del año

diez de la ley trece barra dos mil diecinueve de veintisiete de diciembre por la que se aprobaron los presupuestos generales de la comunidad autónoma para el año dos mil veinte que actualmente asciende a ciento setenta y uno millónes seiscientos cuarenta mil trescientos cincuenta y

millónes doscientos treinta y siete mil trescientos cincuenta y cinco la aplicación de dicho límite

entre los ingresos presupuestados en especial los ingresos de carácter no financiero procedentes de las aportaciones de las diputaciones forales y la evolución real de la ejecución de los mismos por lo que respecta al contenido concreto y pormenorizado de la norma esta se limita a la modificación del artículo

por la que se aprobaron los presupuestos para el ejercicio dos mil veinte ampliando

el saldo del endeudamiento al cierre del ejercicio con objeto de dotar

a la administración de la comunidad autónoma de euskadi con el fin de afrontar

de la comunidad autónoma de euskadi para este ejercicio dos mil veinte en resumen se trata en definitiva de intentar lograr el necesario equilibrio presupuestario para la ejecución

que la financiación necesaria para dicha ejecución se realizará con cargo a las operaciones de endeudamiento para lo cual se prevé la ampliación de límite de la deuda en circulación

esta mayor financiación con cargo a operaciones de endeudamiento con el consiguiente incremento

puede ser razonablemente asumida dada la situación financiera y de solvencia de la comunidad autónoma de euskadi con un nivel de deuda pública en relación al pib

así mismo esta ampliación de la deuda permitirá proceder a cumplir con todos los compromisos de gasto asumidos en los presupuestos aprobados por esta cámara el veintisiete de diciembre pasado y que se han visto acrecentados en muchas políticas públicas por razón

a partir del pasado marzo y de las consecuencias económicas aún más imprevisibles

quisiera referirme al procedimiento elegido por el gobierno para la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley es decir su sometimiento a la aprobación ante el pleno de esta cámara

del reglamento del parlamento vasco el gobierno puede hacer uso sin requerir para ello la previa autorización de la cámara de este procedimiento

así lo exijan circunstancias y razones que concurren en esta ocasión y que justifican la aprobación

del procedimiento de lectura única en efecto tanto el objeto como el contenido de este proyecto de ley justifican su aprobación a través del referido trámite parlamentario

en circunstancias de carácter extraordinario se circunscribe a los límites materiales que señala el reglamento de la cámara y además así lo aconseja la urgente necesidad de su aprobación

finalización del vigente ejercicio presupuestario dado que la formalización y disposición de las operaciones de endeudamiento

del presente año en tal sentido el presente proyecto de ley de naturaleza presupuestaria se limita a modificar el límite máximo

en la ley de presupuestos de la comunidad autónoma de euskadi para el ejercicio dos mil veinte además debe resaltarse la simplicidad en su enunciación y contenido es un artículo único a la naturaleza y sencillez del proyecto de ley se añaden

tales como las circunstancias de carácter extraordinario que han motivado su elaboración

y la revisión de los objetivos de estabilidad presupuestaria acordados como tasas de referencia para la comunidad autónoma de euskadi

así como la urgente necesidad de poner en marcha en el más breve plazo posible las operaciones

habilita por otro lado el proyecto de ley no afecta al ordenamiento de las instituciones de la comunidad autónoma

ni al régimen electoral ni tampoco a los derechos deberes o libertades de la ciudadanía todas estas circunstancias en definitiva aconsejan su tramitación

nosotros nos vamos a abstener pero sí nos gustaría intervenir lo que considere la presidenta

en el turno a favor dónde porque hay gente grupos que van a participar en la explicación de voto

quisiera trasladar en este punto una reflexión que desde vox nos parece importante estamos en un momento de incertidumbre real la segunda ola de la pandemia

más interrogantes que certidumbres más dudas que evidencias la circunstancia es la siguiente el ambiente generalizado entre los ciudadanos vascos es de pesimismo

la incertidumbre sobre la salud colectiva ha saltado hacia la inquietud social

los gobiernos y el nuestro entre ellos han gestionado esta pandemia de una manera nefasta los expertos no existen son políticos llamados a gestionar lo que no saben las evidencias científicas se desvanecen el virus tenía previsto venir con el frío y se adelantó las mascarillas eran la solución y ahora que todo el mundo las lleva

cuando hacían falta rastreadores mirábamos hacia otro lado cuando es necesario un gobierno central fuerte se aparta y traslada toda la responsabilidad a las comunidades autónomas

fija sus recetas particulares más relacionadas con la ocurrencia del momento que con las evidencias científicas la incapacidad política es extraordinaria

es abrumador y la única ocurrencia que se pone sobre la mesa es el peligro de la noche como si estuviesemos leyendo una novela negra y el asesino hubiera sido denunciado en el primer capítulo

vamos a dinamitar un sector económico clave para nuestro país la hostelería y el turismo no podrán sobrevivir pero nos da igual hay que cambiar el modelo

endeudamiento de este gobierno con la limitación de que el saldo al cierre del ejercicio no supere el correspondiente saldo al comienzo del mismo

mil doscientos treinta y siete coma trescientos cincuenta y cinco

la primera consideración es que traen esta cifra pero pudiera ser cualquier otra vamos es esta porque es la que les han autorizado hemos leído que se destinará a salud

atenerse a los hechos lo único cierto por el momento es que hay más cargos públicos lo único anunciado por los diferentes consejeros son más ope más gasto ideológico y ninguna apuesta estructural en las diferentes áreas vamos a mover todo

y los titulares generalistas así lo han recogido azpiazu

sin recortes y lejos de la austeridad azpiazu igualmente ha asegurado que las cuentas de dos mil veintiuno serán valientes sin recortes y lejos de la austeridad

las clases populares los que madrugan para ir a trabajar sus socios de gobierno central no dicen la verdad ni al médico pero centrando el tema qué tiene de malo la palabra austeridad austeridad no significa otra cosa que renunciar

es francamente espeluznante que a los ciudadanos no les quede otro remedio que ser dramáticamente austeros

llevan tiempo en el paro son jóvenes que no encuentran cómo acceder a su primer empleo jubilados con pensiones muy bajas y aquí el agua sigue corriendo ustedes renuncian a esa austeridad cuando gastan el dinero de sus impuestos de los impuestos de los ciudadanos que no llegan al final de mes

y cuando no les llega se endeudan para que lo paguen las generaciones venideras da la sensación de que la incapacidad para afrontar la crisis del covid diecinueve con un mínimo de sentido común les ha llevado a una huida hacia delante cuya única proclama es

como si el señor azpiazu tuviera una máquina de hacer billetes junto a su despacho es inconcebible para el sentido común mientras los ciudadanos no llegan a fin de mes y temen por su futuro

como si no hubiera que devolver las cantidades que se reciben como si no se hipotecaran servicios públicos futuros ante el descenso sin precedentes de la recaudación

ante un panorama desolador de un sector clave para nuestra economía como es la hostelería y el turismo

ni una medida estructural ni una apuesta que no hipoteque nuestro futuro ni una decisión valiente le voy a apuntar algunas medidas que afrontar

antes de hipotecar el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos

fomentar las fusiones municipales otros países muchos más ricos que nosotros lo llevan haciendo hace años reorganizar e i te be una reorganización que conlleve una reducción drástica de su presupuesto

apostar por una arquitectura institucional sostenible y no elefantiasica por ensoñaciones nacionalistas eliminar duplicidades simplificar reducir hacer una administración moderna y no una agenda de colocación en definitiva reformar

no es necesario decirlo pero por si queda alguna duda vamos a votar en contra de este proyecto de ley muchas gracias eskerrik asko martínez andrea

es una pena que el señor azpiazu haya abandonado el hemiciclo se ve que

pero bueno nosotros ya transmitimos en la sesión de investidura nuestra mano tendida al gobierno sobre todo

la economía la recuperación del empleo dentro de la economía también la lucha

de cierto consenso y sobre todo de cierta comunicación que no ha habido nos han traído una propuesta un proyecto de ley de modificación del límite de la deuda básicamente lo que se trata es de ampliar de ciento setenta y tantos millónes que había hasta mil quinientos cuarenta y seis el techo máximo de la deuda es decir que había un desfase de unos mil trescientos

entendemos que es para pagar facturas que ya se han comprometido que ya se han gastado y por eso nosotros por responsabilidad no hemos impedido tampoco tampoco lo habríamos conseguido en tanto que

en este sentido hemos presentado la abstención sobre todo como un gesto de mantenimiento señor azpiazu estaba hablando antes de usted sobre todo como un gesto

esa es la razón por la que nosotros nos hemos abstenido nosotros los presupuestos para lo que se reclamaba un aumento del techo de deuda

por eso por cierto me ha extrañado que se abstengan porque además cuando se trata de incrementar la deuda pues tampoco han puesto nunca muchos problemas pero nos hubiera gustado hablar con ustedes

que lo entiendo eh el trámite de urgencia en estos casos yo creo que es conveniente que los grupos podamos reunirnos primero con el gobierno para que nos expliquen para que nos transmitan ciertos datos que solo tienen ustedes por ejemplo

por qué a fecha de septiembre en el capítulo de inversión solamente se ha ejecutado el veintitrés y pico por ciento son datos que hemos tenido que buscar un poco en irekia es decir simplemente

también a la ciudadanía podríamos incluso haber considerado

el tema de la deuda es un tema siempre delicado nosotros yo creo que aquí sí compartimos un punto en común

la deuda no está para irla engordando sin más sino que la deuda está como una herramienta

sino para coger impulso es por todo esto que

al gobierno en materia económica y de recuperación del empleo especialmente

y si quieren de verdad que podamos encontrar puntos en común y sobre todo usted el otro día decía que quería un presupuesto por unanimidad hombre

a nosotros concretamente con otros grupos pero si quiere de verdad engrasar o sobre todo perdón aumentar los puntos en común pues deben contactar con nosotros para poder discutir estas cuestiones sobre todo cuando en el debate parlamentario esto no es posible porque el trámite

de nuestro voto y por eso yo quería darle señor azpiazu y señorías también la explicación de nuestro grupo muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna

el señor gordillo cuál es la razón por la que nos hemos abstenido bueno ahora si quiere se lo explico

la realidad y por empezar por algún lugar es que hemos pasado de un discurso y de unos argumentarios públicos en relación con prácticamente todos los que administraban

prácticamente como si fuese un dogma de fe el equilibrio presupuestario y la aplicación de la austeridad a un momento en el que parece que el quinesianismo

porque claro ahora mismo con la modificación que viene hoy a pleno en lectura única nosotros dudamos respecto a la voluntad real de que este discurso se traduzca en una realidad es verdad que

exclusivamente la bajada de recaudación el consejero lo ha explicado muy bien pero es que el momento que vimos

del dos mil veinte en este momento fruto de la bajada de recaudación básicamente con la cantidad económica que se ha cifrado para el endeudamiento y para

lo que vamos a a lo que vamos a asistir básicamente es a mantener en términos de gasto las mismas cifras que

que en estos momentos estamos en la segunda oleada de la crisis del covid con la incertidumbre que hay en muchas familias

en muchas pymes con respecto al futuro y con respecto a lo que pueda pasar y con la necesidad de incentivar en la inversión productiva

es verdad que se ha dicho que de cara al dos mil veintiuno va a haber un incremento vamos a tirar de deuda todo lo que haga falta sin abordar por cierto que

en algún pleno de control sin ninguna reforma estructural de la política fiscal que haría

pero en cualquier caso y ahora hablando de cara al presupuesto de dos mil veinte

algo más valientes con respecto a la capacidad de gasto público aumentarlo más allá de la caída de la recaudación pero es verdad que también por sentido de la responsabilidad nos hemos abstenido porque está bien

pero desde luego eso supone que lo que vamos a hacer es una reasignación de partidas que es lo que en su momento también el consejero mencionó en una de sus comparecencias vamos

y ahora las vamos a utilizar para el momento de crisis que vivimos bien ya digo está bien pero eso supone que en algunos aspectos del presupuesto de dos mil veinte aprobado en su momento se van a practicar recortes se van a practicar recortes porque determinadas inversiones previstas en el presupuesto de dos mil veinte no se van a ejecutar para poder ejecutar pues las ayudas económicas

y también las contrataciones en relación con sanidad las necesarias contrataciones en relación con sanidad los cribados masivos refuerzos de plantilla para que eso se ponga en marcha

se ha puesto encima de la mesa es a la bajada de recaudación se va a tener que sacar de otras partidas del presupuesto aprobado en el dos mil veinte pero sí que consideramos que independientemente de eso

y sería asumir la bajada de recaudación sin endeudamiento de cara al dos mil veinte como la realidad lo cual supondría en ese caso sí que dispondríamos aun de menos recursos económicos para hacer frente a esta situación y ese ha sido básicamente el motivo de la abstención en otras palabras y por resumirlo desde nuestro grupo político de cara a este último trimestre

sino que creemos que desde ya se tiene que estar en una política de impulso desde lo público

teniendo en cuenta el procedimiento extraordinario y de urgencia que se ha llevado a pleno es decir que vayamos más allá de sostener el nivel de gasto aumentémoslo esa es básicamente la razón

de que no hayamos apoyado esta propuesta porque desde nuestro grupo político desde nuestra coalición consideramos que se debería haber ido más allá eskerrik asko

de la presidencia desde el escaño los socialistas vascos hemos apoyado este proyecto de ley de modificación de los presupuestos para el año dos mil veinte porque

y legalmente adecuada a los acontecimientos económicos de estas últimas semanas

ejecutando se estableció legalmente el recurso al endeudamiento de conformidad con las previsiones de recaudación por tributos concertados establecidos

además también se tuvieron en cuenta los acuerdos alcanzados entre la administración del estado y la administración autonómica al amparo de lo dispuesto en la legislación en materia de estabilidad presupuestaria y la ley del concierto económico en el establecimiento del endeudamiento tal y como se expone en la motivación del proyecto de ley y tal y como ha explicado el consejero de economía y hacienda la crisis sanitaria y económica que ha provocado la pandemia del coronarias

y a la vez y de forma simultánea se ha producido una menor recaudación por tributos concertados y según las previsiones del consejo vasco de finanzas que se ha celebrado el pasado quince de octubre el cierre de la recaudación por tributos concertados conlleva una reducción respecto al estimado inicialmente

consideramos coherente que los presupuestos se adapten al escenario de mayores gastos y menor recaudación consecuencia de esta pandemia que estamos padeciendo también debemos de tener en cuenta lo acontecido con la comisión mixta del concierto económico en cuya sesión

se acuerda la revisión de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de euskadi y se acuerdan los objetivos de déficit y de deuda al haberse suspendido también las reglas fiscales para el periodo dos mil veinte dos mil veintiuno y ambos porcentajes se han considerado

a estos acontecimientos objetivos públicos hay que sumar la consideración además que los presupuestos deben contribuir a impulsar

desde el equilibrio presupuestario los socialistas vascos compartimos con el gobierno que tanto la previsión de menores ingresos derivados de las aportaciones

del estado y la administración de euskadi aconsejan aumentar el recurso al endeudamiento

con el fin de contribuir a paliar esos mayores gastos y menores ingresos y además a impulsar la recuperación económica y la dinamización de la economía vasca sin perjuicio de mantener ese equilibrio presupuestario inicialmente aprobado

los socialistas vascos hemos apoyado esta modificación del proyecto de ley de presupuestos del dos mil veinte al alinearse con nuestro compromiso de gobierno de utilización rigurosa de los recursos públicos y del endeudamiento de forma responsable para incentivar la respuesta a la crisis económica y del empleo

es que esta propuesta en una u otra medida no deja de ser reflejo de la falta de soberanía de la falta de autogobierno real de este país

hemos escuchado decir que el acuerdo alcanzado en el seno de la comisión mixta del concierto económico y que fijaba este déficit en el dos coma seis es un ejemplo de bilateralidad y autogobierno y décimos que es un ejemplo sí pero que es un ejemplo precisamente de la situación de subordinación

de nuestro pueblo para con madrid porque mire ha sido madrid

los momentos los contenidos y esa cifra final del dos coma seis así que pensamos como digo efectivamente da la medida del nivel real de autogobierno y soberanía con el que cuenta este país es madrid quien decide y por si eso fuera poco nosotros celebramos un acuerdo que en nuestra opinión no deja de ser una birria

con el acuerdo que alcanzó euskal herria bildu con los dos partidos que sostienen el gobierno de españa y que daba la posibilidad de que nos endeudáramos única y exclusivamente como he dicho antes en función de nuestra situación financiera que es qué duda cabe bastante más solvente que la del ebro para abajo y esto me lleva

y es que esta propuesta no deja de ser reflejo también de una forma de hacer las cosas de un modelo de gobernanza vertical y unilateral

que esa cifra tiene que ser del dos coma seis o quién decidió antes que podía ser o debía ser del tres coma nueve con quién hablaron ustedes con nadie más que con ustedes mismos

le diré más si llega a ser el pnv quien llega a alcanzar ese acuerdo al que me he referido antes y no euskal herria bildu sí cuál hubiera sido la actitud de este gobierno sí

por qué este gobierno no defendió ese acuerdo de euskal herria bildu que qué duda cabe era muchísimo más beneficioso que este ustedes han accedido por qué pensamos y lo décimos seriamente y nos preocupa que este gobierno siga sin entender que si ya es poco recomendable actuar y gobernar de esta manera en una situación de estabilidad y normalidad pensamos sinceramente

en torno a que es imprescindible un modelo de gobernanza colaborativa en una situación de auténtica excepcionalidad y ante los retos que tenemos ante nosotros

egun on lehendakari jauna sailburuok jaun andreok egun on guztioi nuestro grupo parlamentario ha votado a favor de este proyecto de ley ya que es un proyecto que tiene un objeto muy concreto y punto que es la ampliación del límite máximo

para el ejercicio dos mil veinte tal y como ha explicado el sailburu

previstos dar respuesta a los gastos adicionales surgidos a consecuencia de esta crisis económica sanitaria

y afrontar la menor recaudación prevista para tributos concertados

lo que tenemos claro es que no es un parche como algunos han indicado es deuda para una política de expansión no de contracción de activación de la demanda de reactivación de la economía

fomentando el empleo y la economía para reconstruir euskadi un proyecto de país que lo necesita ya y de ahí este proyecto de ley y su tramitación por esta vía tradicionalmente es destacable que esta mayor financiación

puede ser asumida dada la situación financiera y de solvencia de euskadi con un nivel de deuda pública en relación con el producto interior bruto entre los más bajos de todas las comunidades autónomas del estado

euskadi se sitúa como la segunda comunidad con el porcentaje más bajo a tan solo cero coma tres por ciento respecto a la comunidad con el porcentaje más bajo

si se adopta esta medida es porque se puede el sistema tiene capacidad gracias a la buena gestión del pasado y el destino dado al superávit en este caso a la amortización de la deuda recordemos que es un destino condicionado por la ley de estabilidad que todos

hemos debido cumplir porque por mucho que se critique la gestión austera del gobierno vasco podemos observar que en aquellos gobiernos locales o forales en los que están o han estado otros partidos políticos en esta cámara todos han cumplido con esta ley y no creo que se les haya tachado de tener unos presupuestos austeros

a su vez de derrochadores ya estoy perdida se habla de neoliberales de verdad pasamos de ser expertos virólogos a ser expertos economistas

volviendo a la referencia de la citada ley de estabilidad y sus limitaciones en cuanto al déficit

un acuerdo histórico conseguido en la reunión del pasado treinta de septiembre la comisión mixta del concierto económico

el concierto económico supone un nivel de autogobierno en materia económica que requiere de respuestas adaptadas a la realidad vasca y así ha sido también en esta ocasión

es un acuerdo bilateral negociado ad hoc para euskadi lo que implica que

es un acuerdo que sienta las bases para el futuro es un paso adelante que nos sitúa en una situación de preferencia

hor daudela las personas que han sido afectadas por un cese de actividad

los momentos iniciales de la pandemia del mundo autónomo percibieron alrededor de seiscientos euros de ayuda por parte del estado como compensación de ese cese de actividad algunas otras ventajas en el sentido de bueno moratorias créditos

los créditos también hay que pagarlos algún aplazamiento y demás pero en todo caso

muy insuficientes para incluso llegar a compensar los gastos hay que tener en cuenta que una persona autónoma

no sufre una pérdida de sus ingresos reales en la misma proporción que bajan sus ingresos brutos es decir si

sea la mitad porque de esa mitad que gana la gran mayoría se va a cubrir los gastos fijos y por tanto ganando la mitad puede darse la situación

directamente cero esas realidades se están dando se están dando realidades que nos comentaban

que teniendo el autónomo que lleva el negocio un cese de actividad y teniendo a uno o dos trabajadores o trabajadoras en erte las personas que estaban en erte estaban cobrando más que el jefe y no minusvaloramos en ningún sentido

aparte de las necesidades de subsistencia personales de él y de su familia o de ella y de su familia tiene además la necesidad de hacer

de su negocio decíamos que el estado había aportado un cese de actividad de seiscientos euros y aquí hemos tenido las ayudas en los tiempos las famosas ayudas de lanbide

algunos errores por parte de los responsables esas ayudas que se concedían por orden de petición con un sistema informático que colapsó y demás pero sí me voy a centrar en la insuficiencia de las cuantías insuficiencia que

por el hecho de que el sesenta por ciento de las personas que solicitaron esas ayudas teniendo el mismo derecho que las que

por el simple hecho de que no había una cantidad de dinero suficiente es necesario por tanto plantearnos el problema en toda su crudeza y también responder en todas las dimensiones de esta problemática eta horregatik guk hemen

en cinco las medidas fundamentales que consideramos a día de hoy imprescindible o bien estas medidas o medidas análogas que ataquen a estos ámbitos y a estas problemáticas para que el sector de la hostelería pueda subsistir porque la situación empeora por días empeora por horas la situación empeora por momentos en primer lugar proponemos que esas ayudas que se dieron en abril y que resultaron

de los solicitantes se recuperen y con los mismos expedientes ya presentados se cree una nueva partida o se amplíe la existente para poder llegar a esas nueve mil personas excluidas a ese sesenta por ciento de personas excluidas

para esas personas son problemas de deudas acumuladas son problemas de que la falta de ingresos se ha traducido

que estas ayudas podrían contribuir a paliar o a tapar proponemos también nuevas líneas de apoyo a las personas autónomas que se vean o bien

actuales o futuras que se puedan dar que evidentemente limitan mucho la entrada de ingresos para aquellas personas que puedan acogerse a las dos modalidades de cese que el estado ofrece

del cincuenta por ciento o superior proponemos una ayuda propia

baremando en función de los bueno de los ingresos que pueda tener el núcleo familiar y de los gastos que puedan existir

que serían compatibles con la ayuda del estado de entre cuatrocientos y quinientos cincuenta por tanto estamos hablando de garantizar un horizonte

como mínimo para las personas que trabajan en el sector de la hostelería y que tengan que cerrar sus negocios repetimos teniendo en cuenta que

también por otra de las medidas que proponemos pero muchos de los gastos seguirán ahí y por supuesto de las deudas contraídas con anterioridad para aquellas personas

vean sus ingresos reducidos en más de un veinticinco por ciento pero no lleguen al cincuenta por ciento del cese proponemos un acompañamiento de entre cuatrocientos y ochocientos euros

bares negocios de hostelería tienen terraza porque se están aplicando nuevas restricciones porque ya no se puede consumir porque no todos tienen no se puede consumir en la barra no se puede consumir de pie antes no se podía ahora tampoco sentados en la barra

limitado de forma brutal y entendemos que incluso pudiendo abrir con estas limitaciones necesitan una ayuda para una apertura asistida de la misma forma que hay que

que sigue abierta porque tiene unos ingresos claramente insuficientes para la subsistencia proponemos atajar la cuestión de los alquileres y ayer con el señor consejero

la idoneidad de las mismas pero en todo caso son unas medidas en vigor que ya están encima de la mesa y son medidas que están bueno traducidas al derecho positivo no son

también contamos y se hizo alusión también en el debate de ayer con la sentencia del juzgado de primera instancia número ochenta y uno de madrid en la que se acepta la cláusula rebus sic stantibus

la cláusula rebus que permite dada la sustancial variación de la naturaleza de la relación contractual permite en el caso de esta sentencia un descenso del alquiler de hasta el cincuenta por ciento pero en todo caso nosotros al gobierno vasco en esta moción lo que le pedimos es que elabore un estudio jurídico para que efectivamente

a posibles recursos para que blinde la fórmula de acceder

una reducción en el pago de los alquileres también proponemos aplazamientos aplazamientos de deudas y aplazamientos de impuestos porque muchas de los aplazamientos que llegaron al principio de la pandemia ahora están cayendo o recayendo

proponemos que se vuelvan a aplazar proponemos que las ayudas sean universales por favor que se dejen de sortear las ayudas que se deje de hacer carreras para las ayudas que cuando unas personas reúnan los requisitos haya una dotación presupuestaria

cuando no entran de lleno en lo humillante pedimos que se agilice la burocracia y sí se puede agilizar hay procedimientos administrativos que mediante una declaración responsable se dan curso y por tanto para estas personas que están ahogadas

a los autónomos durante los tiempos de la pandemia de una asociación de comerciantes que les llamaban profesionales de asesorías jurídicas para preguntarles a ellos qué es lo que tenían que sugerir a sus clientes porque realmente incluso los especialistas estaban perdidos en la materia simplicidad falta de burocracia queremos que cese la estigmatización también de ciertos colectivos que pueden tener su no voy a decir su responsabilidad que pueden tener que asumir

culpabilizados un día sí y otro también como si la pandemia única y exclusivamente

pedimos a los agentes de la autoridad que cuando tengan que cumplir la normativa

de aplicar la normativa entendemos que hay que tener el tacto suficiente creemos que no se pueden precintar los establecimientos de una forma que estigmatice a

marcados y pedimos por último un apoyo al sector al asociacionismo con

tareas de asesoría extra que están haciendo en esta época de pandemia

autónomo del turismo y del comercio para elaborar planes conjuntamente con los responsables de esos ámbitos yo creo que si en este parlamento nos privaran a todos y todas de nuestra fuente de ingresos

o si nos lo redujeran hasta tal punto que no pudiéramos subsistir

no me gusta dar pie a cierta demagogia y a cierta antipolítica generalizada que me parece irresponsable

que si el sueldo y las condiciones de vida que tienen los trabajadores autónomos si los trabajadores

hablamos de comercio hostelería en realidad de autónomos

desde marzo venimos arrastrando soluciones a medias para uno de los sectores que más afectados está por la crisis económica sobrevenida

un sector predominado por autónomos lo he dicho antes que han invertido en muchas ocasiones su patrimonio porque tienen prestamos con las que cumplir mensualmente haya pandemia o no

que tienen un número pequeño de trabajadores y de los que vive la mayor parte de las familias de euskadi nosotros no podemos mirar para otro lado

para no dejar en la estacada a todas esas familias dependientes de un sector tan diverso y enriquecedor que caracteriza tanto a esta comunidad de españa

y a la dedicación que generaciones enteras han prestado a esos negocios euskadi

todos sabemos que aquí se come bien sabemos que aquí tenemos los mejores y más maravillosas parajes del mundo pero qué va a ser de la calidad

que gracias a su esfuerzo han conseguido llevar el nombre del país vasco por el mundo entero

agradecidos a todos esos valientes que durante años han levantado la persiana de sus negocios en muchas ocasiones con el viento en contra pero que no han dejado de preocuparse por sus vecinos no olvidemos que nuestras ciudades sin comercios de cercanía son ciudades sin alma y lo hemos descubierto durante el confinamiento

nosotros estamos en la obligación de dar apoyo económico a quienes durante años se han preocupado de abastecer y de servir a nuestros ciudadanos les voy a poner un ejemplo

es importante en nuestras comunidades en nuestros barrios yo por ejemplo puedo pensar en el panadero que es la única persona que visita la señora la abuela del bloque de al lado que es viuda y no tiene hijos si pasan unos días sin que

barra de pan es el único que va a hacer saltar las alarmas

por este tipo de cosas es por lo que tenemos que seguir manteniendo y dándole

a nuestra economía de cercanía a nuestros comercios de cercanía cuántas veces su dedicación al cliente

en la que la soledad predomina y no me voy a detener en más detalles para argumentar que tenemos que coordinar las ayudas necesarias para que los autónomos accedan de nuevo a las ayudas que se concedieron el pasado mes de abril y mejorándolas

con la que se pueda atender a todos aquellos que cumplan con los requisitos y no sean con un presupuesto que deje fuera de la convocatoria a miles y miles de autónomos que también lo están pasando mal

así como las que pudieran implementar otras administraciones locales tales como ayuntamientos no dejemos fuera de estas convocatorias de ayuda

al que con nuestras medidas para proteger la salud de euskadi estamos arruinando y ayer

pero no dejemos que los autónomos y las pymes de euskadi dejen de abrir sus persianas o por lo menos ayudémosles a mantener el tipo para cuando

las decisiones políticas aunque estén respaldadas por la situación de crisis sanitaria a la que nos enfrentamos

como son los autónomos y en este caso hablamos de un sector muy específico como es el de la hostelería y el comercio y claro claro que es importante que los consumidores lo hagan en las tiendas de barrio que pagan aquí sus impuestos pero no podemos echar balones fuera y pensar

pongamos en marcha cuanto antes las plataformas digitales de las que hace tiempo se viene hablando y demos facilidades al sector del comercio para la digitalización y a los consumidores que ahora no pueden cambiar de municipio para comprar donde más les gusta que puedan hacerlo

hemos presentado una enmienda a la totalidad porque no estamos de acuerdo con varios puntos de la proposición

que para nosotros son fundamentales nosotros apoyamos a las asociaciones de comerciantes

durante el primer confinamiento pero no olvidemos que ahora lo importante es ayudar a los comerciantes y a los hosteleros y destinemos todos nuestros recursos posibles a ellos ahora lo urgente más adelante las asociaciones de comerciantes que no dejan de ser comerciantes asociados

y que su principal fuente de ingresos ha de ser la cuota del asociado segundo uno de los problemas a los que nos enfrentamos nos hemos enfrentado a la última vez es a que las ayudas de lanbide eran incompatibles con las de otras administraciones lo normal

sino complementarias y el tercer punto es que no entendemos por qué hay que castigar a quienes han pagado el impuesto sobre el patrimonio

sus empleados no merecen una oportunidad como el resto el impuesto de patrimonio además en el punto

del ejercicio pasado y por qué no de los cuatro anteriores

la vivienda principal donde se reside puede que eso sea un casoplón como el de galapagar y sin embargo

impuestos no pague el impuesto de patrimonio pero puede que haya gente que tenga una vivienda normal que haya

y que haya tenido que declarar en el ejercicio anterior pues unas acciones unos bonos de los que ahora mismo no puede disponer o no dispone porque están cerrados es decir va a hacer frente a la crisis

la situación especial por lo tanto no nos detengamos

no queremos ayudar o pensamos que son distintos otra vez

por las decisiones que se han visto en la obligación de tomar por lo tanto nosotros apoyaremos nuestra enmienda en la que

sí gracias presidenta saludar también en nombre de los socialistas vascos a los representantes de la hostelería y el comercio que hoy nos acompañan

la interpelación de euskal herria bildu de la que trae causa esta moción planteaba qué va a hacer el gobierno ante la crisis más profunda de la historia del sector comercial turístico y hostelero

doce puntos de ellos solo tres se destinan exclusivamente a lo que es la gestión de la competencia del departamento de turismo comercio y consumo los socialistas vascos junto a los nacionalistas vascos hemos presentado una enmienda alternativa por la instamos al gobierno vasco a mantener

en los presupuestos dos mil veintiuno las líneas de ayudas puestas en marcha en la fase inicial y en la fase de resistencia

como son programas de apoyo a la modernización de establecimientos programa de ayudas destinados a incentivar estrategias zonales de cooperación dinamización

de los productos turísticos de apoyo a los proyectos territoriales turísticos o al emprendimiento y la mejora de la competitividad de las empresas turísticas

instamos al gobierno vasco a poner en marcha cuantos programas sean precisos y viables

también y conforme a lo expresado por el consejero se manifiesta el compromiso del gobierno a analizar y evaluar los resultados de los programas de fomento de consumo

se insta al gobierno a mantener la coordinación y evaluación conjunta con el resto de instituciones de los programas puestos en marcha para ayudar a la sostenibilidad y recuperación del sector del turismo hostelería y comercio

de otras medidas de ayudas que deriven de las buenas prácticas conocidas además instamos al gobierno a seguir colaborando con los representantes

las líneas de colaboración y por último aprovechamos la iniciativa para desde esta institución que es el parlamento vasco reconocer y valorar positivamente muy positivamente el trabajo y esfuerzo desarrollado por los sectores del turismo del comercio y de la hostelería

y por eso instamos al gobierno vasco a promover campañas de reconocimiento del compromiso de los sectores del turismo la hostelería y el comercio

a los efectos de la pandemia covid diecinueve así como el fomento del consumo local las propuestas de euskal herria bildu

además de ser una competencia genérica del gobierno y no del departamento de turismo comercio y consumo quería decirle que ya se han hecho pronunciamientos al respecto y han sido objeto de discusión tanto en la diputación permanente

como en esta nueva legislatura cuando por ejemplo el pasado veintidós de octubre debatimos sobre las medidas urgentes a adoptar en las ayudas extraordinarias para los trabajadores afectados

y aprobamos instar al gobierno a seguir fortaleciendo la mesa de diálogo social para poder concertar la política sociolaboral para hacer frente a la crisis económica y social derivada de la crisis sanitaria mejorando las prestaciones

aprobamos instar al gobierno a mantener las ayudas complementarias a los expedientes de regulación de empleo temporal en las condiciones acordadas en la mesa de diálogo social al entender que ambas figuras son fundamentales en la defensa del empleo durante la crisis permitiendo a las empresas a diferencia de la crisis anterior acudir a mecanismos de flexibilidad y no al despido

en los ámbitos de su responsabilidad van dirigidas primero a priorizar la salud de las personas pero también a priorizar los empleos y su situación económica

y el gobierno y los partidos que sustentamos al gobierno somos plenamente conscientes de esa realidad y porque la conocemos el consejero también lo decía en la

estaban relacionadas con el sector del turismo el comercio y la hostelería el veintiuno coma nueve por ciento de los afiliados a la seguridad social del sector del comercio

en el sector turístico el cuarenta y uno coma ocho por ciento del personal

y en el sector de la hostelería un sesenta y cinco por ciento del personal

estos datos que daba el consejero de turismo comercio y consumo ayer nos sitúan efectivamente en un escenario muy grave que afecta al empleo y a la economía

la caída de ventas en el comercio vasco ha sido de un veintidós por ciento en el segundo trimestre de este año las entradas de turistas han caído un cuarenta y siete por ciento

y la caída de la hostelería se sitúa en un sesenta y cuatro coma tres por ciento en el segundo trimestre de este año del diagnóstico que ayer mismo realizaba el consejero

hay que señalar que tampoco el comportamiento ha sido uniforme dentro del propio sector y ha habido situaciones muy diferentes entre quienes se han visto obligados al cierre y no han podido facturar como en algunos casos ha sido el del ocio nocturno

y entre quienes han aguantado un poco mejor la caída de ventas o de entrada de turistas como los agroturismos

por eso las medidas por eso las ayudas a implantar tienen que ser distintas tienen que adaptarse a las circunstancias y adaptarse a la situación de los sectores y lamentablemente podemos resumir un diagnóstico

el de una situación muy dura muy dura sin duda para sector del turismo del comercio de la hostelería

por eso las medidas que se han implantado las medidas que se van a implantar y que se adaptarán a las circunstancias que se produzcan deben de ser medidas coordinadas deben de ser medidas rigurosas no a la buena pluma porque se nos ocurre y todos somos muy sensibles no tienen que ser medidas rigurosas

entonces implantarla pero desde una coordinación interinstitucional tenemos que aprovechar todos los esfuerzos que están haciendo los diversos niveles institucionales en euskadi

todos los presupuestos y todas las medidas en coordinación y en conjunción para que de verdad podamos entre todos aumentar exponencialmente nuestros esfuerzos

coordinado la situación a veintinueve de octubre de hoy es diferente a la que teníamos en el momento de la interpelación y en el momento del registro de la moción hoy estamos con una declaración de estado de alarma con un decreto treinta y seis barra dos mil veinte de octubre del lehendakari

medidas se imponen medidas específicas de prevención como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica decía el señor casanova no se está haciendo nada sí se están haciendo cosas sí se han hecho cosas por parte del estado se han puesto las medidas a través de un diálogo social de los se han prorrogado erte se han complementado erte por parte del gobierno vasco se han implantado como ayudas extraordinarias por valor de quince millónes de euros ayudas ordinarias por valor de ocho millónes de euros bonos al consumo que salieron del propio sector

pero en conjunto institucional en un acuerdo pionero supusieron y suponen nueve millónes de euros para un impacto de veintiséis millónes de euros se siguen manteniendo las ayudas

es más se han reorganizado diversas partidas para que esas ayudas se incrementen doscientos sesenta y cinco por ciento al sector de la hostelería para las asociaciones

es decir se están haciendo cosas no se puede decir que ni el estado ni el gobierno vasco no ha hecho nada y ayer nos anunciaba el consejero el hecho de crear la mesa interinstitucional en la que estarán el gobierno vasco con tres departamentos el departamento de turismo comercio y consumo el departamento de economía y hacienda el departamento de gobernanza y el departamento de trabajo y empleo

estarán también las diputaciones forales en esa mesa interinstitucional estarán los ayuntamientos de las tres capitales vascas y es ahí con la creación de cinco mesas técnicas de trabajo donde se van a poder hablar de las ayudas de la mediación de los alquileres que era una propuesta que ayer también hacía el consejero

importan al sector son varios temas que importan realmente al sector asuntos de ayudas líneas de subvención

y la agilización de trámites administrativos en todas las administraciones el gobierno vasco tiene propuestas

del sector conoce los problemas está implicado y habrá evaluación de las políticas públicas por si hay que cambiarlas y modificarlas no estamos dispuestos a mantenerlas

se evaluarán y por lo tanto se mantendrán o se modificarán pero creo que el camino serio

interinstitucional de la mano de los sectores más afectados por esta crisis gracias eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak grajales jauna zurea da hitza

beste erakunde askorekin ere creo que ha pretendido usted de alguna manera yo sinceramente eh le agradezco lo que

es urgente las medidas hay que tomarlas ya este gobierno no ha hecho nada y ni siquiera ha tenido el detalle de esperar a presentar

las líneas maestras de su departamento en la que probablemente con otras salidas a la problemática se pueda compartir el diagnóstico y después

que cuando se hacen que cuando se hacen de antemano en cualquier caso

del consejero no vivimos un momento en el que hay que discernir muy bien qué es lo urgente qué es lo importante y en este momento debemos hincarle

a lo que es urgente pero sin perder en ningún caso de vista lo que es importante porque no solo se trata de salvar el presente de nuestro comercio

de prepararlo también para las situaciones que puedan que puedan venir en un futuro no nik uste dut eta ez dut berriro azalduko

baina premisa faltsu bategatik hasten zinen ezta no es que este gobierno en este gobierno no ha hecho nada en los últimos meses

suele recordarnos escenas de cine muchas veces en esta cámara a mí me recordaba un poco a aquella escena de me acordaba esta semana de la loretta de la legislatura pasada

hasta que vi a loretta con john klisch al lado en una sala oscura

dice bueno pues aparte de lo que ya había el gobierno vasco ha sacado quince millónes de euros a través de lanbide de los cuales

ordinarias adaptadas a las nuevas circunstancias bueno pero aparte de lo de lanbide y de los ocho millónes en ayudas ordinarias

otros en coordinación con otras instituciones ha puesto cinco coma siete millónes de euros creo que eran de un total de nueve de los que se espera

de veintiséis no además de un incremento en subvenciones asociaciones federaciones plataformas etcétera etcétera pero claro los romanos

dicen que llegamos tarde claro menos mal iríamos mucho mejor

estaríamos mucho mejor y en mucha mejor disposición de enfrentarnos de enfrentarnos

en cualquier caso en cualquier caso este es el momento de resistir de empujar de ayudar a que las graves consecuencias de la pandemia puedan ser limitadas al máximo pero también es momento de tener mirada larga como decía para encarar el futuro es el momento de tomar decisiones en coordinación en cooperación

con el conjunto de las instituciones para evitar duplicidades y para afinar el objetivo compartido de salvar al sector es momento de medidas estructurales

el mantenimiento de las estructuras empresariales hay que impulsar medidas para fomentar la liquidez de las empresas y sobre todo para evitar la destrucción

y la activación del consumo local el compromiso debe empezar por uno mismo por una misma debe ser individual

y desde el punto de vista institucional hay que tomar decisiones sobre fiscalidad sobre tributos sobre ayudas a fondo perdido sobre créditos avalados que posibiliten la pervivencia del sector

sobre trámites administrativos etcétera etcétera etcétera pero desde el realismo la capacidad de cada administración y con el único objetivo de intentar acompañar de manera leal al sector porque usted sabe señor casanova que esas medidas incluidas todas las que usted ha traído hoy aquí

no solo ya del departamento de consumo turismo y comercio sino ni siquiera del gobierno vasco por eso en la opinión de nuestro grupo es un cierto la reunión de la mesa interinstitucional

usted nos ha traído medidas con un presupuesto ilimitado destinadas no solo a los sectores que nos ocupan hoy sino a todos los autónomos lo cual me hace pensar que usted sabe que lo que plantea en los términos estrictos en los que lo plantea en su moción son imposibles de cumplir usted hoy

ante terceros en nuestro no y a mí ya lo sabe no me importa que venga y nos haga la trampa de hacer la moción para

no me importa ni siquiera me importa que usted nos traiga hoy propuestas que exceden no solo a la capacidad de este gobierno

a la de cualquier otro me temo no me importa que nos haga trampa a nosotros me importa que les haga trampa y les engañe a ellos a estos señores que están aquí arriba a esos me preocupa que les haga trampa que pretenda hacerles creer que

a la frustración que es lo único que necesitamos en la lucha contra la pandemia porque además no necesitan falsos paternalismos

sin dormir pensando en el futuro de su negocio y de su gente y aun así se levantan todas las mañanas como decía ayer

para hacer frente a su futuro y mantener el empleo de sus trabajadores y trabajadoras

ni falsas expectativas necesitan la verdad enfrentar la realidad tener espacios en los que puedan aportar sus soluciones y su punto de vista y trabajar con certezas si alguna certeza se puede tener en estos tiempos y porque es nuestra gente es nuestra familia son nuestros amigos y amigas es nuestro pueblo seguiremos trabajando por y con ellos

por telle por todos ellos y ellas seguiremos trabajando para ayudarles desde nuestro compromiso individual

a todos la hostelería no vive en la incertidumbre sino en la certeza de la quiebra ya era hora de que se tratase este tema aquí ya era hora de dar cuenta

obligan a aceptar a los sectores del comercio y turismo

en chivo expiatorio no lo entienden ellos y no lo entendemos muchos aplaudimos muchas de las medidas que han presentado aquí todos los grupos parlamentarios en la oposición pero dada la nueva realidad de la política vasca parece que el parlamento es simplemente ornamental las medidas las toman unos y los restos

no se habría tardado más de medio año en reunirnos aquí para tratar de solucionar la situación la política tiene unos ritmos lentos la ciudadanía en general esto lo comprende pero en este caso es inaceptable recordaba ayer el consejero

y cuál fue la sorpresa de todos cuando descubrimos que las cosas aún van a tardar más

y nos invitó a esperar a la creación de una mesa interdepartamental para dar nuevas ayudas que se reunirá

no lo podemos entender oiga yo regento un negocio y les puedo constatar en primera persona cuál es la situación de la incertidumbre absoluta en la que nos encontramos todos

no hay diálogo lo que hay son tomas de decisiones unidireccionales y lentas muy muy lentas señores del gobierno hablan de dos tiempos resistencia e impulso de acuerdo pero tenemos al paciente en la uci necesita ya la medicación en la crisis el cómo como el cuándo no es un capricho de la oposición de verdad que no lo es el panorama es desolador no habrá impulso que dar si el paciente no llega vivo a febrero

nuestras medidas se basan en un principio básico de resistencia pero somos muy honestos

ni los empresarios pueden prever lo que va ocurrir de aquí en adelante

veremos cómo apañar la cuestión de los alquileres señores del gobierno la cuestión es sencilla ponen el dinero encima de la mesa o no resulta que hay dinero para obras faraónicas para mayor gloria del pnv como por ejemplo el tav

treinta millónes de euros que este parlamento seamos serios lo gasta diariamente

diciendo que vamos a salvarles la vida sabiendo que no es así pongan los recursos encima de la mesa o el resto como he dicho es propaganda

esa apelación que vimos ayer a la responsabilidad individual para hacer que los ciudadanos compren en el pequeño comercio frente a las grandes plataformas como amazon porque no pagan impuestos

o no hay nada que hacer con el voluntarismo no hacemos nada absolutamente nada

un comerciante necesita como mínimo para subsistir un treinta por ciento

no puede hacer absolutamente nada contra el doce con el que juega amazon cuál es la propuesta taparles los ojos a los consumidores para que no vean que el pequeño comercio no es competitivo

en vox queremos jugar con las mismas leyes jugar con las mismas posibilidades no pedimos migajas pedimos igualdad de oportunidades no por capricho sino por convencimiento

por diferentes portavoces un diagnóstico o un pequeño diagnóstico sobre el impacto

y hostelería negocios de toda índole que están subsistiendo a duras penas estos meses a causa de la crisis motivada por la pandemia y sectores en los que sabemos también que están sufriendo la crisis de manera especial

específica debido también a la particular afección que sobre ellos tienen las necesarias medidas para reducir el contacto social y también la movilidad las cuales como sabemos se han tenido que endurecer esta semana

la sensación que algunos nos transmitían hace no tantos días era que en euskadi las cosas no estaban tan mal y esto va a suponer un nuevo golpe también en estos

y la vida con la defensa de la actividad económica generadora de riqueza siempre desde la base de que la salud y la vida son lo fundamental en un debate que también ha estado ahí estos meses en la sociedad pero esto es válido independientemente del sector económico del que estemos hablando si es importante

que lo es lo es también hacerlo en otros lugares como por ejemplo

donde nosotros pensamos que no se está haciendo de la misma manera y donde pensamos que tal vez estos sectores ven un agravio comparativo en el autobús por poner un ejemplo en el que podemos venir de donostia a gasteiz los jueves día de pleno

permítame la expresión como sardinas en lata mascarilla sí pero distancias de seguridad no por supuesto nada de hidrogeles y por supuesto nada de aforos

decimos esto porque pensamos que la sensación que en ocasiones nos transmiten quienes viven del comercio y la hostelería sobre que las medidas adoptadas para cortar la transmisión del virus están muy enfocadas o directamente relacionadas con el ocio suponiendo para estos sectores un mayor perjuicio que para otros debería ser abordada en nuestra opinión

el último punto de la enmienda de los grupos que apoyan al gobierno que vaya por delante que nosotros compartimos esa declaración sino que tiene que ser completado primero que eviten esa sensación de posible discriminación por ejemplo teniendo el mismo nivel de exigencia en las medidas de seguridad en el transporte público y segundo y es el debate que tenemos hoy en este punto con medidas concretas y potentes de respaldo para garantizarles que aun en esta complicada situación

medidas que pasan sin duda por las ayudas directas pero también por acciones destinadas a mantener cierta capacidad de consumo dirigida de manera especial al comercio y hostelería local para lo cual también nosotros no vamos a dejar de citar que se deben de cuidar las políticas que eviten disminuciones salariales en otros sectores de la economía pensamos que esta es la mejor receta para que quienes viven del comercio la hostelería

sean también mejor entendidas por la sociedad y por quienes viven directamente de estos sectores

afectan a todos los sectores pero sabemos que las destinadas a disminuir la movilidad y el contacto social están teniendo una incidencia directa y específica en el comercio turismo y hostelería y sobre esto hay que actuar si las indicaciones sanitarias nos llevan a un necesario escenario

lo lógico es habilitar las medidas concretas que eviten esos impactos que nos lleven a un escenario donde alguien pueda interpretar que la defensa de la salud pública y la defensa de la economía en estos sectores

a los autónomos y a las empresas que pasen por dificultades de continuidad real las importantes medidas puestas en marcha por el gobierno de españa en este sentido han evitado en nuestra opinión un desastre total durante la primera ola de la pandemia

y ante esta segunda oleada todas las medidas que se hayan tomado hasta la fecha han de ser al menos reforzadas desde mi grupo parlamentario elkarrekin podemos izquierda unida hemos sido muy críticos lo saben ustedes en relación a las ayudas a los autónomos puestas en marcha por lanbide

y se tuvieron que corregir algunas cuestiones más bien chapuceras ya lo dijimos en su día pero no queremos volver sobre esto para convertirlo

en medio ya de esta segunda oleada mi grupo puede ser más o menos crítico también lo explicité ayer en la comparecencia del consejero

también sobre las cantidades destinadas a las ayudas pero más allá del debate sobre si la cantidad de dinero dedicado por el departamento al apoyo a estos sectores en esta situación

lo que sí debería ser al menos un denominador común entre el gobierno

es que se hace necesario redoblar esfuerzos para salvar el mayor número de puestos de trabajo en estos sectores y cuando hablo de puestos de trabajo en esta ocasión no me estoy refiriendo exclusivamente a las y los trabajadores asalariados las previsiones en el corto plazo ya se ha dicho también no son halagüeñas para los sectores del comercio el turismo y la hostelería

porque esta segunda oleada que ya está aquí puede suponer el mazazo definitivo para muchos la iniciativa que se nos plantea que trae a debate euskal herria bildu

en ese sentido y además concreta de una manera bastante gruesa el cómo hacerlo por esa razón nuestro grupo no ha hecho ninguna enmienda y va a votar afirmativamente

más allá de que algunas nos parezcan más necesarias que otras o que podamos hablar sobre las diferentes cantidades que se podrían destinar a unas

no voy a esconder que en esta cuestión nos hubiera gustado un acuerdo entre quienes traen la iniciativa y los grupos que sustentan al gobierno hubiera querido decir entendemos que se acuerda una iniciativa para mejorar el respaldo que necesitan estos sectores ante el impacto de la crisis aunque no hubiera sido en los términos cantidades

el señor casanova es cierto que el pnv y el partido socialista presentan una enmienda que habla de incrementar económicamente las ayudas a través de los distintos programas existentes nosotros valoramos positivamente esto hablan también de puesta en marcha de nuevos programas en este sentido

otras medidas perdón de apoyo a los sectores de los que hablamos valoramos también

pero no es menos cierto que no concretan cómo ha de ser ese incremento

de las nuevas ayudas por eso pensamos que la diferencia entre las dos opciones la del grupo proponente y la de los grupos que apoyan al gobierno está en la concreción

siempre ha sido partidario de concretar de alguna manera los mensajes que el parlamento

de proposiciones no de ley o en este caso de mociones es cierto que la enmienda de los grupos que apoyan al gobierno no incluye cuestiones que nos parezcan especialmente criticables y que además apunta en una dirección que no nos parece contradictoria

casanova pero obviamente y una vez que no hemos presentado una enmienda propia desde nuestro grupo desde luego nos vamos a quedar con una iniciativa que concreta las medidas yo no sé si la iniciativa que trae el señor casanova ha sido realizada

sus preocupaciones y su trabajo previo en este parlamento

la intervención del señor grajales por algunas de las cuestiones que él ha mencionado pero no voy a entrar a ello porque como le digo su enmienda

especialmente criticable pero que no concreta las medidas así que nosotros lo que vamos a aprovechar también hoy aunque se lo dije de alguna manera ayer también

aunque sea un debate entre grupos uno de los principales argumentos

es que hay que hacer las cosas de manera coordinada que hay que esperar que hay que evaluar se lo oímos ayer al consejero hay que evaluar lo que se ha hecho hasta ahora muy bien nosotros desde luego no nos oponemos a eso pero sí que queríamos lanzarles este mensaje

han podido tener su impacto y habrá que valorarlo pero ese impacto de la primera ola en estos sectores está todavía actuando duro sobre ellos

por lo tanto aunque no sea en general buen consejo las prisas creemos que sí que hay premura en esta cuestión y le pedimos les pedimos premura en esta cuestión nada más eskerrik asko

representante del partido popular querría decir que a pesar de que ha manifestado que se van a abstener en la votación de nuestra moción nosotros nosotras sí vamos a votar a favor de la suya de hecho

de hecho da la impresión de que yo he hecho el noventa y cinco por ciento de su enmienda en todo caso aunque falte alguna cosa creo que

como para votar a favor y sobre el impuesto de patrimonio hombre

más una excluida la vivienda habitual yo creo que esas personas

no necesitan ayudas necesitan que les demos la enhorabuena porque les ha ido bien en la vida

parecido simplemente la necesidad de que las ayudas los apoyos las prestaciones

o sea que ahí no hay discusión señor grajales a ver

complemento de una buena comida y el suplemento de una mala pero no se puede decir lo mismo de la vida de brian no tome usted las citas de la vida de brian en vano

pero no trate de esconder su carencia argumental con esas citas porque no queda bien

usted está debatiendo también porque le están escuchando aquí presentes y fuera de aquí las personas directamente afectadas y sí le voy a dar otra cita de cine

a quién van a creer los autónomos y los hosteleros a usted o a sus propios ojos a usted o a sus cuentas corrientes eso que dice de los romanos si nos han dado millónes esa lluvia de millónes usted cree

si ustedes creen que no se ha podido aportar más díganlo si ustedes creen que no hay margen presupuestario díganlo si ustedes creen que las prioridades son otras díganlo pero no digan que han aportado de forma suficiente para satisfacer las necesidades de los autónomos y de la hostelería

que está agonizando en términos económicos qué van a pensar de usted van a pensar pues eso que todo el resto que ha dicho de que propongo cosas que no son competencia que hago trampas

de su argumentación es un lugar común decir que claro todo lo que propone eh bildu son pájaros y flores que los serios son ustedes solo ustedes saben gobernar que lo demás son ensoñaciones que tratamos de engañar a la gente de crear falsas expectativas nafarroa

ilimitado con el partido socialista gobernando sabe lo que hizo su partido cuando presentamos esta propuesta

porque ya habíamos hablado del tema de los autónomos y evitar que se debatiera dos mil doscientos euros para todos ilimitado también son ensoñaciones está en vigor y se ha pagado no como ustedes que hicieron

limitada de la propuesta supongo que votarán a favor no creo que les haya convencido

y por tanto esa enmienda será aprobada una enmienda que habla

de esta enmienda y de la comparecencia de ayer del señor consejero las propuestas concretas y materiales para incrementar las ayudas de apoyo a la hostelería se resumen en esto cero euros a día de hoy no sabemos lo que dará de sí la semana que viene en la comisión

para excluir a eudel no vaya a ser que se cuele algo de cierta pluralidad en ese tipo de comisiones que tanto

al parlamento y a los agentes del sector a los del sector que parece que no tienen

en este tipo de cuestiones ustedes han decidido a día de hoy incrementar en la cuantía de cero euros las ayudas al trabajo autónomo

al sector lo que le importa que estaba agonizando lentamente hace tres semanas y que está empezando a agonizar rápidamente ahora lo que le importa es la materialización de las ayudas concretas

gracias voy a empezar por hablar de la enmienda

ustedes quieren mantener lo creado hasta ahora

y sin palabras rimbombantes y voy a ser muy clara estamos hablando del plato de alubias

que los estudios y los informes no les van a pagar ni su comida ni sus viviendas y menos los sueldos de los trabajadores que puedan tener a su cargo y

claro que es dura pero la verdad la verdad es que si quieren se les puede ayudar

lo que pasa es que no hay voluntad real no perdamos

ahora lo urgente es que esta gente no tenga que cerrar la persiana para siempre y

cortar pon las tuyas a remojar y ayer escuchamos al presidente francés macron confinar de nuevo a la población

más severas porque el toque de queda no ha funcionado pues miedo me da que dejemos de ser previsores para lo que pueda llegar aquí ojalá no

pero cuáles son las previsiones que tenemos para mantener a nuestro comercio a nuestra hostelería y a nuestros autónomos

de ayudas para los autónomos y resulta que estamos hablando

seguir con el negocio quiere mantenerse tiene que hacerlo pero dónde están ustedes

sí gracias presidenta mire señor casanova los socialistas

el consejero de turismo comercio y consumo en una sesión en la que vox no estuvo presente y lamentamos no haberle podido escuchar porque ayer no tomó la palabra al no estar presente pero quería decirle que el gobierno está trabajando

con el sector de la hostelería con el sector del turismo y con el sector del comercio y

desde el primer día se ha trabajado desde el primer día de la pandemia quiero decir y desde estado de alarma

hemos estado en diputación permanente tratando medidas de apoyo para los sectores más afectados entre ellos esos la hostelería el turismo y el comercio

nada nos es ajeno de lo que se ha dicho aquí cómo no compartir un diagnóstico de la gravedad de la situación pero no se puede decir que ha habido cero euros porque eso es mentir eso es mentir y desde el primer momento cuando desde el gobierno de españa se adopta a través de la mesa de diálogo social se adopta con los agentes sociales

la prórroga de los erte y en el gobierno vasco se adopta el complemento de los erte y la prórroga de ese complemento de erte no se puede decir que no se ha puesto un euro

un euro desde eso desde lo de ayer hasta hoy

va a los sectores del turismo no no eso no es ayer eso no es ayer las ayudas no se consumen

esos quince millónes de ayudas extraordinarias al sector de la hostelería y al sector del comercio son para cinco mil cuatrocientos empresas del sector del comercio y de la hostelería

ustedes traen aquí una propuesta que podía haber tenido quince puntos más quince puntos más lo que me extraña es que se haya quedado en doce y usted sabe que cuando quiere acordar

sí señor casanova usted sabe que trae una propuesta para quedar bien para decir que ustedes son alternativa de no se sabe muy bien qué pero eso no es la verdad de lo que está ocurriendo

está poniendo más de treinta millónes sobre la mesa para intentar paliar en la medida de lo posible estas circunstancias tan nefastas para los sectores del turismo el comercio y la hostelería

la situación desde el día del lunes no es la misma que la del jueves pasado no es la misma son otras circunstancias por lo tanto otras medidas habrá que implantar y para eso es fundamental la mesa interinstitucional y no se equivoque señora larrea no estamos desplazando en el tiempo el asunto creo que ha sido usted si no me disculpa creo que ha dicho

se crean cinco mesas técnicas para los asuntos que realmente importan

a esas personas que están en el sector del comercio de la hostelería porque estamos en la fase de resistencia

los negocios porque estamos convencidos de que hay que mantener los empleos porque si no hacemos si no llegamos a realizar bien

no habrá posibilidades de hacer la fase de reactivación de impulso y de dinamización será imposible y nadie más interesado en que estos sectores

estatus de su actividad que el consejero de turismo comercio y consumo que asiste a las reuniones del labi para enterarse y para dar a entender cuáles son las inquietudes las necesidades que tienen estos sectores que son de los más afectados él es el interlocutor entre el sector o los sectores y

por lo tanto aquí nadie está cruzado de brazos aquí está poniendo todo el mundo la carne en el asador estamos dispuestos a modificar propuestas

entre todos y de la mano y con la mano de los sectores afectados para salir adelante

y que no sabemos cómo va a acabar pero desde luego que nadie se lleve a engaño aquí se está trabajando con propuestas concretas sobre la mesa nada estamos inventando nada estamos dejándolo al albur del ya veremos qué pasa no no no

con ciertas certezas y con muchas garantías porque para eso está el gobierno vasco

y el grupo que le sustenta y también creo que nacionalistas vascos para hacer esas políticas de progreso y de mantenimiento de la actividad de sectores muy afectados nuestra solidaridad cuentan con nosotros si hay alguna cuestión que consideren que tienen que hablar estamos a su entera disposición lo saben de antemano pero se lo digo desde esta

está con ustedes reunido habitualmente pero en la medida en que necesiten al partido socialista y al grupo socialista cuenten con nosotros muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea disculpen si les llamo caballeros pero es que no les conozco demasiado bien

o aquella que decía citadme diciendo que me han citado mal que es lo que acaba de hacer el señor casanova darle la vuelta a lo que yo he dicho quizás precisamente

porque le faltan argumentos para defender las heridas de su propuesta

no sé si era de groucho aquella también que dice si eres capaz de seguir hablando continuamente al final te saldrá algo bonito algo divertido y la gente se acabará riendo

no es el caso señor casanova mire yo no he dicho en ningún momento yo no he dicho en ningún momento que con el dinero que ha podido sacar este gobierno con las ayudas de lanbide

hayamos llegado a todo y que la situación sea maravillosa no yo he dicho que partíamos

en todo este tiempo haciendo otra cosa es que a usted no le guste

es suficientemente clara cuando dice en su primer punto que para dos mil veintiuno

cinco planes que ya están en marcha van a digamos ver incrementado su presupuesto

al gobierno que incremente que saque nuevas líneas de ayuda que busque

de colaboración con otras instituciones para poder mejorar la situación porque las medidas que usted traía hoy aquí y a eso tampoco me ha respondido tienen que ver con este departamento no solo tres de doce algunas tienen que ver con otros y otras tienen que ver con otras instituciones qué

las instituciones afectadas que aquí no hacemos brindis al sol que aquí trabajamos

dice la propuesta no se concreta yo le prometo que nuestra propuesta se va a concretar en la actividad del gobierno y en los presupuestos del dos mil veintiuno y dice voy a votar hoy la del señor casanova porque el señor casanova es conocido en esta esta cámara

el otro día el señor casanova explicó en rueda de prensa su iniciativa primera pregunta de la periodista o del periodista fue han valorado

estas medidas concretas cuánto suponen y de dónde se va a detraer ese dinero porque ya saben ustedes que los presupuestos no son esto lo añado yo

ahí desde el escaño y tal es bastante complicado sabe cuál fue la respuesta del señor casanova dice no

exactamente lo mismo que acaba de plantear la señora de vox quiero decir esto es serio

pues le ponemos un lazo al país y lo tenemos perfecto verdad pero igual tener tren de alta velocidad también podría ayudar al comercio al turismo como lo han hecho otras infraestructuras a las que estos señores y señoras se han opuesto históricamente en cualquier caso no pasa nada

la vida de brian de hecho estoy convencido de que usted es el mesías y de eso entiendo mucho porque he seguido a varios

mistoa martínez andrea bertatik lo hago desde el escaño señores del gobierno

después de escuchar al pnv en su exposición parece que han estado repartiendo felicidad al sector muchas ayudas van a repartir

hostelero a hostelero si las ayudas que prometen y han prometido les han llegado les aseguro que se llevarán una triste noticia es más señor consejero
me presto a ir con usted y ver el resultado muchas gracias eskerrik asko martínez andrea elkarrekin podemos

un poco por cortesía aunque a algunos les pueda parecer curioso con el partido popular porque no

a la que pues hemos estado dudando si íbamos a votar a favor o abstenernos porque es verdad como ya se ha dicho pues que es una enmienda casi idéntica que presenta el grupo proponente pero una de las diferencias

que la señora larrea ha planteado es precisamente con el tema de excluir de esas ayudas a quienes hayan tenido que pagar el impuesto de patrimonio una cuestión con la que nosotros sí estábamos de acuerdo

de incluir ese asunto planteaba otra manera de hacerlo

varios periodos impositivos y quiero decir esto porque bueno finalmente vamos a votar también a favor

en realidad estamos de acuerdo con ello pero en esto pues nos llama la atención

ustedes capaces también de acordar entre dos grupos de la oposición es verdad que nosotros no hicimos enmienda pero nos parece que

hay algo peor que es que existen todavía vetos entre grupos políticos para no presentar una enmienda transaccional donde prácticamente